jarduten du el trabajo de esta oficina de la infancia y de la adolescencia desde una perspectiva cuantitativa

expedientes de queja tramitados treinta y tres de ellos de oficio y en múltiples colaboraciones con organizaciones sociales y en participaciones en foros de encuentro y debate sobre la mejor manera de proteger

esto supone alrededor del trece por ciento del total de los expedientes de queja que tramita nuestra institución estas cifras que acabo de dar

no incluyen aunque esto merece ser tenido en cuenta quinientos setenta y seis reclamaciones que estaban relacionadas principalmente con el sistema vasco

y que son también susceptibles de afectar a menores que corren el riesgo de encontrarse en situación de penuria económica

la conmemoración del veinticinco aniversario de la formación por la asamblea general de las naciones unidas del convenio sobre los derechos del niño ha estado presente de manera constante en la actividad de la oficina

niñas y adolescentes en situación de precariedad económica en euskadi nos lleva a recordar que primero los derechos proclamados por el convenio

por ello actuar para garantizar unas condiciones de vida dignas

vulnerabilidad es una cuestión de derechos no es una cuestión

la experiencia en segundo lugar de la crisis económica ha afectado casi

al principio de igualdad de oportunidades cuando el efecto protector e inclusivo de las políticas públicas se debilita las personas que parten de una situación de desventaja tienen dificultades para salvar las distancias

y se traslada de generación en generación romper con la desigualdad es en este caso de nuevo

de derechos hablar en todo caso del convenio es destacar el papel protagonista de sus titulares las niñas niños y adolescentes quienes son auténticos sujetos de derechos tienen voz propia y reclaman espacios de participación

desde esta institución hemos asistido con una cierta preocupación a la existencia de diferencias que mantienen los principales agentes educativos con respecto a la puesta en práctica de los proyectos presentados en el marco del plan

a esto se suma lo hemos constatado un fuerte rechazo suscitado en nuestra comunidad

por la entrada en vigor de la ley orgánica ocho barra dos mil trece

a nuestro modo de ver sería deseable buscar el máximo consenso en torno al modelo educativo propio

de la escuela pública vasca en este sentido lo que respecta al apartado de admisión del alumnado

reiterativos creemos que se debería abordar una reflexión en profundidad sobre los criterios prioritarios que son aplicados en los

en particular sobre el criterio referido a la proximidad del domicilio familiar debido a la utilización abusiva de los datos del padrón

sin que hasta ahora se hayan tomado contra ella medidas

en cuanto a la planificación educativa es ineludible que los responsables continúen con la línea ya emprendida de propiciar y favorecer la planificación democrática

nos parece irrenunciable evaluar la aplicación del plan estratégico de atención a la diversidad

lo que contribuirá evaluar la aplicación de este plan lo que contribuirá a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado con dificultades educativas especiales cuya situación es motivo

repetidas por parte de las familias afectadas en el ámbito de la sanidad y el derecho a la salud la reforma del real decreto dieciséis barra dos mil doce

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad

siendo fácil en un contexto de competencias compartidas a ello debemos añadir la necesaria toma en consideración de decisiones adoptadas

desde otras administraciones exteriores a las sanitarias

y en particular con los permisos de residencia

es preciso intensificar el apoyo institucional a las entidades

y que persiguen mejorar la calidad de vida de las personas

diversos e importantes avances en el desarrollo del espacio socio sanitario

cuanto antes el proceso de aprobación de la cartera de servicios socio sanitarios y los mapas correspondientes

la implantación de una estructura común para los planes operativos territoriales

su especial vulnerabilidad y la dificultad que sufren para el acceso a los recursos públicos

de los derechos de los que son también titulares esto exige impulsar actuaciones que permitan su efectiva integración

el sistema de garantía de ingresos se ha consolidado en estos últimos años y también lo fue en mil novecientos catorce

garantizar la cohesión social y la dignidad de las personas que residen en nuestra sociedad el equilibrio social es a nuestro juicio

la protección social es a la postre una fuente de riqueza a la que no podemos renunciar

dos mil catorce quiero decir el sistema vasco de protección social ha sido objeto

se ha destacado la información relativa al origen nacional de las personas beneficiarias sobre otro tipo de consideraciones

y se ha creado una amalgama desafortunada einfundada que vincula injustamente creemos prestaciones sociales con fraude

no están en la mayoría de los casos relacionados con la existencia de fraude y esto se infiere del análisis de las quejas que hemos tramitado las numerosísimas quejas que hemos tramitado

son a nuestro juicio casos aislados que no reflejan la realidad de las personas que habitualmente solicitan prestaciones ni su situación de pobreza la mayoría de las personas que han presentado quejas en este terreno

simplemente de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas

los requisitos o las obligaciones que lanbide exige

que son las que permiten poder beneficiarse de estas prestaciones como ya se señalaba en dos mil trece lanbide

y en materia de vivienda se constata mayor agilidad en cuanto a plazos de resolución se constata también una disminución de los retrasos para resolución de los recursos

mucho en la mejor motivación de las resoluciones insistimos en la importancia de preservar mantener

como en la general que se deriva de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

también nos parece importante que se regule un régimen adecuado de infracciones y sanciones en el que se tipifiquen detalladamente las conductas

y se prevea un régimen de prescripción teniendo en cuenta entre otros los principios básicos del derecho sancionador y sobre todo el principio de proporcionalidad

la suspensión o extinción del derecho a la prestación únicamente debería imponerse cuando haya una pérdida o ausencia de requisitos

a la prestación dispone de ingresos para hacer frente a sus necesidades más básicas el resto de los incumplimientos y obligaciones deberían dar lugar

y no a la suspensión o extinción del derecho las administraciones públicas vascas deben asumir con responsabilidad

a la promoción de la autonomía personal y a la protección de la dependencia priorizando en todas sus políticas la atención a este colectivo especialmente vulnerable para ello resulta clave establecer niveles adicionales de protección

que se nos ofrece con la aprobación del decreto de cartera de servicios sociales para paliar el retroceso que se ha producido en el plano estatal y garantizar una efectiva aplicación de la ley de servicios sociales del país vasco y constituir una clara expresión de la competencia exclusiva

social de la que disfruta nuestra comunidad es preciso señalar que la discapacidad reduce la capacidad económica no solo de quien la padece sino también de su entorno familiar

una serie de gastos adicionales que limitan su renta real disponible

ese mayor esfuerzo económico que tienen que realizar las personas con discapacidad para poder incorporarse a la sociedad y participar en ella de una manera normalizada la crisis financiera y económica ha tenido un fuerte impacto en muchos hogares

que tienen miembros en paro o bien carecen de ingresos las personas inmigrantes se encuentran en situación mucha veces de mayo vulnerabilidad en comparación con las familias autóctonas

destaca como elemento emergente sumamente preocupante la pobreza infantil de los menores extranjeros en este sentido las políticas sociales

la situación de vulnerabilidad o dificultad o necesidad social con independencia de otros factores como es el origen de las personas o su situación administrativa

por otro lado la estigmatización de las personas gitanas sigue siendo una barrera que obstaculiza su promoción social económica y cultural

y al mercado de trabajo todavía son muchas demasiadas las personas gitanas que viven sin un alojamiento adecuado agua luz y otras carencias de necesidades básicas

o de situaciones discriminatorias o vejatorias contra su dignidad

debemos trabajar para cambiar los valores sociales y hegemónicos y aceptar la diversidad sexual y emocional los chicos y chicas y utilizando el acrónimo lgtbi

y los hijos e hijas de familias monoparentales deben tener las mismas condiciones y oportunidades en la escuela y en la sociedad

dignidad autoestima y seguridad y evitar que se conviertan en invisibles en euskadi el apoyo público a las familias se ha orientado a la dotación de recursos y servicios comunitarios de proximidad

o los centros de día para las personas en situación de dependencia sin embargo las autoridades y las administraciones vascas deben reforzar también

familiares que son merecedoras de especiales recursos o protección con objeto de crear un marco unificado para los titulares de derechos de las medidas dispuestas por las diferentes administraciones este es por ejemplo el caso de las familias monoparentales

el año pasado hemos tenido todos que lamentar

violencia de género los asesinatos sucedidos en euskadi de mari luz alejo rodríguez y su madre amelia rodríguez en abadiño

ha de evaluarse de forma exhaustiva lo sucedido analizar qué puede ser mejorable en términos de protección policial y social

para evitar la repetición de casos trágicos como los que acabo de mencionar

de la cultura el arte y de ciertas prácticas deportivas

en este sentido los alardes de irún y hondarribia siguen siendo espacios

subsisten las desigualdades sin que las instituciones públicas concernidas actúen con la determinación necesaria

insistir en que los poderes públicos deben favorecer con medidas de acción positiva las iniciativas de defensa del derecho de igualdad de las mujeres

hay que resaltar que la vulnerabilidad de las personas que sufren enfermedad mental se manifiesta de forma particularmente aguda en su relación con el sistema judicial penal y la estancia en prisión así lo puso de manifiesto el informe extraordinario del ararteko

en la comunidad autónoma del país vasco que se debatió en comisión muy recientemente al mismo tiempo

la existencia de ventajas de grandes ventajas del nuevo modelo asistencial

en materia de salud implantado en dos mil trece que define el

como una parte más de la estructura global de la asistencia sanitaria

la mediación sigue representando uno de los ámbitos que más noticias positivas produce en materia de justicia habiendo destacarse

la fuerte irrupción del derecho colaborativo un método alternativo de resolución de conflictos

una de sus herramientas y en cuya aplicación euskadi está siendo pionera

son desgraciadamente insuficientes para poder atender adecuadamente el nivel de demanda provocado por las actuales circunstancias socio económicas lo que requiere esfuerzos suplementarios por parte de las

seguimos constatando en tema de vivienda una amplia brecha entre la demanda y la oferta

los poderes públicos deben adoptar medidas normativas y económicas enérgicas para una efectiva garantía

la aprobación reciente de la ley de la vivienda que garantiza la exigibilidad del derecho a la vivienda ante los tribunales

por parte de las administraciones públicas vascas especialmente si se quiere dar la respuesta efectiva

en régimen de alquiler del análisis de nuestras intervenciones en dos mil catorce se observa que las administraciones públicas vascas están tomando conciencia de la relevancia que tiene para el desarrollo de una vida digna

y en este sentido se han adoptado medidas positivas para contener el precio de los alquileres y evitar que las dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias

de una vivienda de protección pública la coordinación entre las administraciones públicas con competencias en el área de vivienda y de asistencia social continúa resultando imprescindible para evitar situaciones de exclusión residencial

en el ámbito de la función policial debo decir que es esta una de las

porque tiene por objeto garantizar el ejercicio de derechos y libertades por parte de la ciudadanía

queremos en consecuencia recalcar y agradecer la labor que realizan

así como los de las policías locales que son las policías sobre las que el ararteko

cuestiones que son recurrentes como el uso de la fuerza su control interno la investigación interna de actuaciones incorrectas o supuestamente incorrectas el control de los atestados en cuanto a los hechos que los motivan

en la vía pública el registro corporal durante la detención las detenciones por simples faltas o incluso por hechos que no son

el abuso de autoridad y la negativa de ciertos agentes a facilitar su número de identificación personal

que adopte medidas para prevenir y controlar la elaboración de perfiles raciales

por considerar que tal manera de proceder primero no sirve a los objetivos de prevención de delincuencia en segundo lugar carece de justificación

tiene una naturaleza discriminatoria en materia de medio ambiente y para promover y proteger el estado

de salud y el bienestar de la ciudadanía hemos propuesto a las administraciones competentes aprobar las medidas adecuadas en los términos de la directiva marco del agua

de las aguas destinadas al consumo humano conforme al objetivo estratégico de fomentar los espacios de participación y diálogo con la sociedad civil

en el ámbito del control ambiental por ejemplo con la creación de la mesa sobre petronor sobre el derecho al acceso a la información medioambiental

la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información

por la ley reguladora de los derechos de acceso a la información medioambiental veintisiete barra dos mil seis

en materia de medioambiente en lo que respecta a los derechos lingüísticos

quejas en determinados ámbitos específicos señaladamente el policial el judicial y el sanitario pero debemos

la mejoría observada en la gestión por parte de los poderes públicos concernidos

y se han adoptado nuevas herramientas de planificación que incorporan algunos de los criterios que esta institución del ararteko

en esta materia en materia de deporte insistimos en una obligación fundamental

participan en el terreno del deporte escolar tanto públicas como privadas

con un espíritu de participación y un espíritu educativo que es el que ha de inspirar

a estas edades ararteko erakundeari eman zaion

señoras consejeras señor lehendakari este es el

el señor manu lezertua como ararteko aunque corresponde al trabajo realizado por su antecesor el señor iñigo lamarca ya que corresponde al ejercicio

todas las bondades del mundo y toda la suerte en lo personal y mucho acierto en lo profesional esperamos que efectivamente le vaya muy bien

desempeños aunque no se trate de hacer un análisis de los datos recogidos en el informe sí llama la atención el brusco descenso de las quejas recogidas en este año seis mil trescientos setenta y ocho respecto a las

el treinta y cuatro por ciento menos si bien es cierto que en cuatro años anteriores el porcentaje de quejas duplicado debido fundamentalmente a las relacionadas con el pésimo funcionamiento de lanbide ahora disminuye porque este organismo va poco a poco mejorando sus prestaciones aunque desde luego le quede mucho para ser plenamente satisfactorio como decíamos el año pasado el informe del ararteko es un reflejo de lo que está

a la institución es una consecuencia directa del grave momento de crisis económica y de los efectos provocados en la ciudadanía sobre todo en los más desfavorecidos por la aplicación de las políticas gubernamentales de recortes sociales y de derechos

sobre el que nos corresponde la labor fundamental de control se podría destacar que el ochenta por ciento de las quejas abiertas se refieren a las áreas sociales es decir inclusión

vivienda y sanidad fundamentalmente el área de inclusión social sigue siendo el que acapara el mayor número de quejas ciudadanas el cincuenta y uno coma cinco por ciento

vivienda con el nueve coma cuarenta y uno por ciento y sanidad con el ocho por ciento si bien se observa que inclusión experimenta una bajada de diez puntos respecto al año anterior todas las demás suben un uno coma cinco por ciento y un tres por ciento aproximadamente son ya varios años los que lanbide y el caos que se generó tras la asunción del pago de las prestaciones sociales de la renta de garantía

y de sus informes en el informe del año dos mil trece ya se destacaba la mejoría en la prestación del servicio

pero eso no nos puede hacer ser complacientes porque el año pasado se plantearon aún nada menos que quinientos setenta y seis quejas por el mal funcionamiento de lanbide el noventa y seis por ciento de todas las que se presentan en el área de la inclusión social como años anteriores el mayor número de quejas se produce por la denegación o extinción de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda destacando que en el último trimestre del año se incrementaron las quejas por las masivas

por lanbide por cantidades abonadas de manera indebida tema en el que este parlamento ya se ha pronunciado y ha exigido

un sistema de devolución que no perjudique a los perceptores de esas ayudas sociales teniendo en cuenta que estamos hablando de los eslabones más frágiles de la sociedad de las personas que están en situación de alta vulnerabilidad el hecho de que sigan presentando tantas quejas

es ciertamente preocupante me gustaría destacar una frase de la memoria que tiene que ver con un debate que hemos mantenido y repetido en este parlamento durante los últimos tiempos

no están relacionadas con la existencia de fraude como se infiere de las quejas que hemos tramitado y del análisis de las mismas

aislados y no reflejan la realidad de las personas que solicitan estas prestaciones

de pobreza no es nueva la recomendación y se vuelve a repetir este año la de que se regule el régimen de infracciones y sanciones y lo que nos parece más importante y vuelvo a citar textualmente la suspensión del derecho a la prestación únicamente se debería acordar cuando hay una pérdida temporal de requisitos de tal manera que se garantice que a la persona que se le suspende el derecho a la prestación

a las necesidades más básicas y nos sumamos a la crítica que deja entrever el ararteko al señalar que el nivel de intermediación laboral conseguido por lanbide es bajo más bien podríamos decir que es prácticamente nulo ya que este organismo en este momento se dedica casi en exclusiva

y prácticamente nada o muy poco a la labor de intermediar entre empresas y demandantes de empleo desde luego

escasos y pobres resultados el incorrecto funcionamiento en estos capítulos genera grave indefensión en el afectado lo que a todas luces es censurable y deberíamos exigir a la administración una acción rápida y contundente para evitarlo no olvidemos que suele ser una persona con graves dificultades por lo que no es de recibo

además le ponga más problemas en el campo educativo coincidimos plenamente con el ararteko cuando demanda un mínimo consenso en torno al modelo educativo

a conseguir como viene siendo habitual en estas intervenciones nos centraremos también en el área de vivienda que afecta también directamente a las personas más vulnerables

la aprobación de la ley de vivienda debe venir acompañada de un importante esfuerzo presupuestario por parte de las administraciones públicas vascas

una respuesta efectiva a la creciente demanda de vivienda protegida en régimen de alquiler esto es lo que dice el informe y lo que nosotros reivindicamos si comparamos el proyecto de presupuestos del año dos mil dieciséis con lo presupuestado en los últimos años y en concreto en el último ejercicio observamos cómo el incremento en materia de vivienda

a dos millónes de euros con lo cual queda muy en evidencia o muy en cuestión el compromiso de este gobierno con el cumplimiento efectivo y real de la actual ley de vivienda lo cierto es que se siguen destinando ingentes cantidades de dinero para asuntos que podrían ser considerados muy menores

un asunto fundamental como es el tema de la vivienda digamos que no se dota presupuestariamente de manera suficiente al menos así lo vemos nosotros

por parte del gobierno vasco en los últimos tiempos que la aplicación de la ley de vivienda tendría un efecto casi catastrófico en el proyecto de presupuestos futuros

en el proyecto de presupuestos del ejercicio dos mil dieciséis con lo cual podríamos concluir que este gobierno no tiene voluntad de hacer cumplir y cumplir

el parque de viviendas protegidas y que deben reforzarse los programas públicos de captación de viviendas libres para su alquiler social señala el informe acertadamente

y la cumpla y destine en los presupuestos las cuantías que sean necesarias como digo es un asunto esencial para la ciudadanía para finalizar con la memoria del año dos mil catorce haría una referencia al capítulo de víctimas del terrorismo para hacer una aclaración dice el informe que desde el cese de la actividad armada por parte de eta no se ha producido ninguna vulneración del derecho a la vida

y a la seguridad personal de los ciudadanos por actuaciones de grupos terroristas es cierto que al no haber actuado directamente ningún grupo terrorista no se han producido esas vulneraciones pero no cree que todavía falta mucho para recuperar la libertad plena en euskadi nosotros creemos que sí

el gobierno que hay un entorno de esos grupos terroristas que sigue coartando

de los que no piensan como ellos nosotros pensamos que sí

que debemos decirlo y denunciarlo estamos de acuerdo con el informe cuando señala que en el ámbito municipal resulta preciso que se realicen actuaciones de reconocimiento

a los más de trescientos casos de personas asesinadas por la banda terrorista eta pendientes de resolución le decíamos

ararteko debería dedicar una parte de sus esfuerzos a reclamar a las instituciones a las administraciones que este asunto no caiga

satisfacción a las víctimas en su reclamación de justicia verdad y reparación como digo y como vengo repitiendo en los últimos años son más

pendientes de resolución sin embargo en el informe no se dice nada sobre este asunto voy a finalizar también con un clásico

que le hacemos de redimensionamiento de la institución seguimos considerando que no es de recibo ni la estructura ni los niveles salariales existentes

de la institución del ararteko más allá de la reforma legal que se llevará a cabo en breve en este parlamento pensamos que hace falta un compromiso claro

objetivos dicho todo esto señalo también lo que habitualmente señalo el ararteko presenta anualmente su informe en ese informe se ponen de relievo determinadas actuaciones de los diferentes gobiernos y el modo en que están sufriendo muchos ciudadanos de a pie

de corregir todo ello el responsable último o los responsables últimos de hacer la vida mejor y más justa al conjunto de la sociedad son los gobiernos y somos también los representantes políticos somos los responsables de resolver los problemas reales

atender especialmente a los ciudadanos más vulnerables y atender sus reivindicaciones en materia de políticas sociales dependencia educación

es por lo tanto cuestión como siempre de voluntad política nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andreak dauka hitza

a últimos de dos mil catorce es decir del año de

se nos acaba de informar se iniciaron los trámites parlamentarios por iniciativa del grupo popular de una proposición de ley de regulación de la institución del ararteko para adecuar y dimensionar su estructura y acomodar

control y austeridad que exigen los ciudadanos a los que sirve el ararteko esperemos que ello se materialice antes de finalizar la actual legislatura coincidiendo con la nueva etapa

sería un buen comienzo porque también en dos mil catorce ha finalizado el mandato señor lamarca tras diez años al frente de esta institución

se ha conmemorado el veinticinco aniversario tiempo suficiente para que el ararteko se haya afianzado en el acervo ciudadano de la cultura cívica de los vascos el ararteko es un referente y una garantía para salvaguardar los derechos de los ciudadanos vascos

que usted afronta su nueva responsabilidad en un momento de inflexión y con un horizonte diferente en muchos sentidos al de su antecesor

usted nos ha dado en su exposición el debido cumplido del informe anual de dos mil catorce en una intervención que si se me permite la metáfora musical sincopada puesto que ese año usted no era el ararteko en cualquier caso

está dedicado a las actuaciones del ararteko en defensa de los colectivos de atención pública con once apartados quisiera detenerme en el apartado once para empezar que es el que se dedica a personas víctimas de los grupos terroristas el estado de ánimo que nos embarga tras los atentados de parís

de eta que hemos sufrido los vascos en su informe se dice textualmente que resulta reseñable que la falta de actividad terrorista desde que en dos mil once eta declaró el cese definitivo de la violencia ha supuesto que no se ha producido ninguna vulneración del derecho a la vida

y a la seguridad personal de los ciudadanos por actuaciones de grupos terroristas dice también que es necesario que las instituciones vascas

a la reparación a la justicia y a la verdad de las víctimas del terrorismo durante el año dos mil catorce no se han recibido quejas en relación con el área de personas víctimas de grupo terroristas aun así le ánimo

que merece la atención y actuación de su institución independientemente de las políticas públicas que tengan lugar por otras administraciones entidades otra cosa el grupo popular no lo entendería

en democracia el respeto y la trascendencia de entonar y escuchar la marsellesa dignifica a los ciudadanos

su vida por acción de los terroristas que desprecian la democracia los diez apartados restantes del capítulo

están dedicadas a las actuaciones del ararteko en defensa de colectivos de atención pública

que quisiera reseñar por la incidencia que tiene en las políticas de los diferentes gobiernos del país vasco sería el caso de la familia la familia debe ser protegida por los poderes públicos

por eso se debe prestar más atención a las quejas relativas a los retrasos en las ayudas por hijos e hijas y ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral también hay que mencionar a los numerosos ciudadanos y ciudadanas que se han quejada con motivo de la finalización

también desde el grupo popular queremos recordar al gobierno que hay personas que se están viendo excluidas de la percepción de estas ayudas

y se excluyen no porque quieran sino por dificultades de tramitación en la solicitud algo que las administraciones y el gobierno debería facilitar

no se deben pasar por alto las recomendaciones para desarrollar políticas

reforzar las inversiones públicas conciliar vida familiar y laboral también por la incidencia que tiene el envejecimiento poblacional y en el sistema de bienestar

vulnerabilidad en cuanto a la igualdad e integridad de las mujeres la violencia de género vemos por desgracia que tampoco desaparece del informe de dos mil catorce siendo una preocupación prioritaria con margen de mejora en el informe del ararteko en particular se apunta a mejorar el personal del sistema de justicia

otro colectivo son las personas con discapacidad que siguen quejándose del incumplimiento de la normativa de accesibilidad en instalaciones y edificaciones

que haya quejas por la falta de accesibilidad en dependencias administrativas y en centros de salud

pública que javier gomá analizó también en su ensayo no es de recibo que las administraciones públicas

las personas con enfermedades crónicas deben ser necesariamente atendidas por las administraciones públicas vascas y se manifiesta una vez más la insuficiencia de recursos especializados como en el caso de las personas afectadas por daño cerebral desde el ararteko vemos como se informa a las personas con enfermedad mental o trastornos mentales

sin cuestionar los criterios técnicos médicos que esos

no puede intervenir las personas en prisión también han tenido una atención preferente por parte del ararteko y su intervención y mediación han tenido resultados satisfactorios con quejas solucionadas relativas al disfrute de beneficios penitenciarios y el desarrollo de actividades culturales

adolecen de problemas y manifiestan quejas fundamentalmente relacionadas con la suspensión de prestaciones sociales de contenido económico con las relaciones de convivencia y con la denegación de la inscripción en el padrón esperemos señor lezertua que estas quejas no acaben siendo crónicas

personas inmigrantes y diversidad cultural es un apartado también específico del informe

inclusión social educación vivienda sanidad y seguridad quisiera destacar aquí la apelación que nos hace el ararteko a la tradición humanista europea y a los derechos humanos universales es importante destacar que en dos mil catorce no se ha registrado ninguna queja tramitada en el apartado de

y personas transgénero y transexuales además tenemos que felicitarnos todos y subrayar lo importante que es que el ararteko haya coordinado el proyecto europeo rainbow que tenía como objetivo principal y la mejora de la situación de los derechos de la infancia y adolescencia a la diversidad sexual en el ámbito educativo previniendo y combatiendo las actividades

a las personas mayores y personas en situación de dependencia se rige por lo heterogéneo y cada vez más numeroso colectivo de personas mayores de sesenta y cinco años

han sido encauzadas a través de diferentes administraciones pero pueden manifestar una necesidad como en lo relativo al traslado de un territorio a otro en el seno de la comunidad autónoma del país vasco de la persona en situación de dependencia beneficiaria de plaza residencial o

y la atención a la situación de dependencia aquí es donde se habla precisamente y lo ha mencionado el señor lezertua de la carta de servicios sociales como una oportunidad

dan para mucho siendo las relativas a prestaciones sociales de contenido económico las principales

y llega a la conclusión de que la actuación administrativa no ha sido correcta dirige una recomendación o sugerencia por ello tengo que referirme

de estas recomendaciones y sugerencias y en concreto quiero señalar las relativas al gobierno vasco lamento destacar el departamento del señor toña

y diecinueve que no se han aceptado digamos que si hacemos un balance de las quejas y recomendaciones y sugerencias que se hacen

las que han sido aceptadas y las que no su departamento de acción social y empleo es el que arroja un saldo negativo a su favor en detrimento de los ciudadanos también en su descargo diré que hace referencia al dos mil catorce año en el que usted no era

cuestión merecería una mayor reflexión del gobierno vasco y más receptividad hacia quienes controlan la acción del gobierno en materia social y laboral cuando hablamos de lanbide y presentamos medidas para mejorarla y de la gestión de la renta de garantía de ingresos que nos avala también este informe del ararteko hay que reconocer que la lectura del informe anual no nos deja

y en cuanto a las administraciones públicas afectadas a todos los niveles autonómico

que tire la primera piedra que hay para todos no siendo un barómetro sociológico es un catalizador social enriquecido con informes sectoriales jornadas y seminarios todos ellos de gran interés social y de gran sensibilidad como los relativos a la infancia y la adolescencia en situación de precariedad como ha dicho el señor lezertua es una cuestión de derechos y no de caridad por eso debería ser una obsesión para este gobierno acabar infantil de la que habla también este informe finalizo recordando de nuevo a nuestros vecinos de francia país de las luces y de los derechos humanos

colgada en la página web del ararteko ilustres intelectuales franceses fallecidos recientemente como

y antes stéphane hessel no han podido vivir para ver

y dado que es la primera vez que se presenta ante este pleno quisiera reiterar

al señor lezertua que fue nombrado ararteko en mayo de este año

el informe de dos mil catorce que hoy se nos ha presentado corresponde al último año en el que ejerció de ararteko el señor lamarca

de ritmo de trabajo de situaciones a las que atender estamos seguros que la línea de servicio a la ciudadanía que siempre ha inspirado la labor del ararteko va a continuar

e implantada posteriormente en otros países según han ido alcanzando madurez democrática tiene como principales objetivos

y los y las ciudadanas intentando se dé respuesta a las quejas que estos pueden tener en su relación con aquella informar a la misma ciudadanía sobre sus derechos

sobre irregularidades que se puedan cometer realizar análisis de diferentes realidades sociales

actuar como observatorio social para detectar nuevas necesidades de los ciudadanos en relación con nuevas realidades económicas sociales o políticas todas estas funciones son las que caracterizan al ararteko como una institución que intenta salvaguardar los derechos de la ciudadanía

un plus de democracia lo que podríamos decir es que avala una democracia de calidad las diversas actuaciones del ararteko se van incrementando año a año y yo creo que fundamentalmente es por tres razones una son las propias necesidades derivadas de las condiciones socioeconómicas

como instrumento válido por los ciudadanos para resolver sus quejas

proactiva y preventiva en muchos casos ante situaciones sociales nuevas es la tercera de estas razones

incremento del número de asesoramientos esto es algo que se viene repitiendo desde los primeros años de actuación del ararteko y que se ha visto reforzado con el estallido de la crisis económica

la inmensa mayoría se refieren a quejas informaciones y asesoramientos las quejas relativas a las prestaciones sociales previstas para luchar contra la exclusión social son las que mayor peso tienen pero también otras áreas como educación vivienda o sanidad recogen buen número de estas quejas

a la que se dirige la queja es el gobierno vasco el receptor de la mayoría con un sesenta y dos coma once por ciento seguido de la administración local con un veintisiete coma noventa y dos por ciento y ya más alejada la administración foral

las reclamaciones se presentan preferentemente en la oficina del ararteko teniendo también una fuerte presencia de internet también se puede resaltar que el número de visitas

por territorios es de resaltar que en araba con una población sensiblemente inferior a la de gipuzkoa por ejemplo se presentan más quejas que en esa provincia de

se resuelven con la simple intervención de la institución lo que nos da una idea de la eficiencia de la misma

valoración de la intervención setenta y dos coma veintisiete por ciento muy buena o buena posibilidad de recomendación a otras personas sesenta y tres por ciento en todos los casos estos datos demuestran

y referente imprescindible en materia de defensa de derechos humanos y hablando de derechos humanos me gustaría resaltar para que se tenga en cuenta para próximas actuaciones de la institución dos aspectos que están de suma actualidad estoy seguro que sobre estos asuntos que voy a comentar todas las personas que trabajan en la institución del ararteko están perfectamente sensibilizadas

la crisis sigue azotando y sus efectos siguen plenamente vigentes en nuestra sociedad

la pobreza en todas sus manifestaciones es cada vez mayor personas mayores que tienen que complementar su pensión

hogares que no pueden encender la calefacción o que no pueden acceder a cualquier otro consumo de energía

a esto se le añade una situación que hacía generaciones que no conocíamos personas con trabajo con salario indecente que no pueden cubrir las mínimas necesidades

y del ejecutivo pero el ararteko puede cumplir una función de denuncia de situaciones y de control que será muy provechosa la otra cuestión que me gustaría comentar

es el crecimiento en nuestras sociedades de actitudes intransigentes y xenófobas

en áreas geográficas no tan lejanas están produciendo una avalancha de personas

en nuestro entorno toda la sociedad debemos responder ante este problema posiblemente el más importante que se nos plantea

atentados territorios que denunciamos como los ocurridos en pasado viernes en paris

contra los refugiados o contra migrantes que viven entre nosotros actitudes xenófobas las hemos conocido el martes mismo

para denunciar y rechazar rotundamente las pintadas que han vuelto a aparecer en la sede de la asociación afroamericana de vitoria

los poderes y representantes públicos tenemos que mantener una actitud firme contra estos brotes violentos y en este caso también el ararteko

también quiero referirme a las víctimas de violencia de género lacra social que debemos evitar entre todos si queremos solucionar para finalizar quiero desear
éxito en su desempeño al ararteko así como a todo su equipo muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

esaten zuen aurreko arartekoak hay que actualizar las políticas sociales porque la situación es nueva ados honekin baina gu bezala

no existe referencia zenuen zuk ararteko jauna aurreko batzordean estamos trabajando con tema de presos con enfermedades crónicas irrecuperables

sobre la supervisión de la actuación de las administraciones públicas en el ámbito del país vasco en educación se hace mención expresa a la preocupación

promovida desde algunos sectores ya que la misma no está exenta de riesgos que además afectan directamente a nuestros y nuestras menores postura que compartimos en este grupo todo posicionamiento en contra de la lomce debe ser consensuada

con la suficiente seguridad jurídica para el alumnado las familias el profesorado en lo referente a la inclusión social queremos traer a colación

que se recogen en el informe anual porque es un tema que preocupa y ocupa a este parlamento y sobre el que nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones y leo el sistema vasco de garantía de ingresos reduce tanto la extensión como la intensidad de la pobreza de las familias

continua distintas encuestas e informes avalan la mejor situación de nuestra comunidad autónoma con relación a otras por disponer de un sistema de protección social más dimensionado los presupuestos

siguen siendo una prioridad de las administraciones públicas vascas que están haciendo un esfuerzo importante para su mantenimiento y estoy leyendo literalmente

también se habla de las mejoras producidas en lanbide a pesar de que oídos los discursos de otros representantes parece que todo está fatal pues

visitas a las oficinas de lanbide en el mes de mayo visitamos varias oficinas de lanbide de los tres territorios históricos el objeto de las mismas era conocer su funcionamiento de primera mano y poder valorar los avances realizados desde que hicimos las anteriores visitas en verano del año dos mil doce la valoración que hicimos fue de una clara

observados tales como citas de atención por el personal de lanbide mejora en los tiempos de espera

procedimientos administrativos que se siguen derivados de la gestión de las prestaciones de rgi

actuaciones desarrolladas dentro de las denominadas políticas activas de empleo

etcétera se aprecian claras mejorías por lo tanto pongamos en positivo también las cosas que existen porque si no nos queda la sensación de que todo está fatal

eman beharko litzaioke indarrean dagoen zigor kodeari se menciona expresamente la preocupación por la gran incidencia y nefastas consecuencias

se ha presentado esta misma semana en la comisión de derechos humanos el informe extraordinario del ararteko titulado la atención sociosanitaria la salud mental de las personas privadas

ez naiz luzatuko y respecto al informe anual de la oficina de la infancia y de la adolescencia

y que tan solo un dos por ciento son presentadas por los propios menores amaitzeko berretsi gure esker ona arartekoari giza eskubideen defentsan